presidenta señorías lehendakari le interpelo como usted ya lo conoce sobre esa conversación que tuvo con

a finales del mes de junio más específicamente pregunto un poco sobre cuales han sido las conclusiones prácticas de aquella conversación si usted recuerda y por lo menos así se publicó

compartía con el gobierno de españa la prioridad en la lucha contra la crisis económica que compartía que había que trabajar comúnmente

y además señaló que había un amplio campo de entendimiento entre ambos gobiernos en estas materias esto fue a finales de junio de entonces a aquí ha pasado

yo también por eso he esperado a preguntarle a interpelarle a este respecto porque en este tiempo ha habido muchos sucesos de carácter

y parece razonable que estas materias las hayan abordado y sobre ellas también tengan algunas conclusiones

algunos de estos asuntos que son los que me gustaría que hoy nos pudiera decir alguna cosa tenemos en materia económica

entendimiento en materia económica tenemos el cupo del año dos mil catorce tenemos también el cupo del año dos mil quince

ambas han sido unilateralmente abordadas por el gobierno de españa doblando lo que era ese abono de cupo a la comunidad autónoma vasca por lo tanto ahí tenemos un problema de carácter económico dentro del plano económico está el objetivo de déficit

a este respecto yo le estoy planteando que el gobierno vasco

negociar para discutir con el gobierno de españa un déficit diferente usted sabe que eso no sería nada del otro mundo es decir que esto se hace usted sabe que el gobierno de españa que tiene que marcarse un objetivo de déficit con la unión europea

para establecer y ordenar ese déficit público entre el conjunto de las administraciones entre ellas la administración vasca usted sabe además que hay diferencias entre administraciones a la hora de plantearse ese objetivo de déficit más allá de si luego

otra cuestión por lo tanto también esta es una materia económica en la que usted algo tendrá que decir algo habrá hablado

tal campo de entendimiento y relación económica

obviamente habrá algún planteamiento que hacer está la liquidación del cupo que como sabe esto ya traspasa a distintos gobiernos llevamos siete años aproximadamente

sin haber efectuado esa liquidación de cupo y ahí también hay

una cantidad de recursos en el plano del empleo

fruto de esa reunión usted hizo una cita en la que decía que era una de las prioridades sobre las que había hablado en ese plano sabe que

vamos muy lentos más allá de lo que significa el proyecto en sí mismo como sistema de comunicación pero usted sabe

con una capacidad de inversión por parte o con una disposición de inversión por parte del gobierno de españa muy

influye sobre el empleo y si estamos hablando del empleo esta es una buena forma de reactivar el empleo hacer inversiones

bastante de las ope aquí también se ha señalado por alguno de los miembros de su gobierno que las ope están contando también con una dificultad por legislación básica para tratar de poder desarrollarlas

que tendría que desbloquearse obviamente esto tendría que haber formado parte

dentro de la política de empleo habrá que recordar el desmantelamiento progresivo del aeropuerto de foronda por citar una de las infraestructuras que tiene esta comunidad y que también afecta el empleo fíjese el descenso de empleo desde la plantilla antes de esa reconversión forzosa que hizo el gobierno de españa a la actualidad por lo tanto me imagino que esto también sería una materia de preocupación y de intentar resolverlo porque obviamente

que son comunes no hace falta inventarse los problemas están sobre la mesa y hay que buscarles soluciones en el plano de los presupuestos generales del estado como usted bien sabe a parte de que

las inversiones en relación con la investigación cae también en picado en la disposición económica para otras actividades por ejemplo

entre otros muchos en el campo de la cultura el descenso es también extraordinario yo quisiera saber quisiera saber dónde esta ese campo de entendimiento si tenemos unos presupuestos en los que euskadi

si tenemos un cupo unilateral que nos dobla la aportación que tenemos que hacer si tenemos un objetivo de déficit

de poder generar economía y empleo si además las inversiones que están en marcha se frenan si en las ope se pone todas las dificultades para que no salgan adelante en fin quisiera

y que haya tantos problemas y que no sepamos todavía cuál va a ser su desenlace pues yo creo que es un motivo de preocupación para usted en primer lugar porque es la máxima responsabilidad en este país pero para todos los demás porque también queremos que este país funcione por lo tanto yo como creo que he apreciado también según sus palabras de aquella reunión que la discreción y la lealtad iba a presidir su relación con el gobierno de españa

cuando afecta a cuestiones de la ciudadanía de la sociedad no lleve a la ocultación yo creo que no hay

hablar sobre estos temas como hay que hablarlo es evidente que usted tiene la obligación de defender el autogobierno de desarrollarlo y estas

materias de desarrollo del autogobierno y materias del desarrollo de nuestra actividad socioeconómica según se cuenta porque yo allí no estuve pero usted sí estuvo tres horas de reunión y efectivamente en tres horas hay mucho tiempo para hablar

usted en total no empleó tres horas y estaba hablando de todos los problemas del país vasco bueno

con el gobierno de españa imagino que estos asuntos estarían bien tratados tendrían alguna expresión que usted hoy nos podrá contar también en aquella reunión usted habló de la necesidad de convocar la comisión mixta del concierto para abordar el cupo no sé si ha habido algún encuentro igual el mejor lector que tiene en su gobierno de periódicos

que nos lee y sabe todo lo que se publica pero yo no he visto nada a riesgo de que me pueda reñir luego el señor erkoreka porque igual

para tratar este asunto ve cómo leo los periódicos ha dicho que no que no los había leído bien por lo tanto se habla de que

hay muy buen clima y muy buena comunicación y yo me alegro muchísimo de que usted tenga tan buen clima y tan buena comunicación ya ve usted que esto de los amores va por barrios ahora le toca al barrio del señor urkullu tiene buen clima buena relación con el pp con ese pp

son cosas íntimas pero ya que tiene tan buen clima y tan buena relación

que antes de salir a la tribuna y antes de escucharle a usted estaba perplejo con la lectura de su interpelación

con su exposición iba a aclarárseme esa perplejidad o alguna duda pero estoy sumamente perplejo después de su interpelación manifestada verbalmente en esta tribuna y no sé cómo contestarle

y verbalmente aquí lo ha hecho usted hacía referencia

a finales de junio mire que usted lo tenía fácil porque en mayo fue cuando yo solicité una reunión al presidente del gobierno español

y en septiembre me reuní con él pero en junio

no pasó nada y he tenido que acudir a la hemeroteca para descubrir también en esa perplejidad en la que estaba ante lo que era la interpelación planteada por usted y verbalmente expresada ahora

hacían referencia en realidad a la primera reunión de enero de dos mil trece a la primera reunión de enero de dos mil trece nada más y nada menos por lo tanto

ha llegado con casi dos años de retraso en cualquier caso quiero ir a lo positivo y atender lo que ha sido el tono de su intervención y el contenido de su intervención con el ánimo además

de aclarar la preocupación que usted pueda tener pero reconózcame por lo menos que yo pueda estar perplejo por las exposiciones de la interpelación y las justificaciones tanto por escrito como verbalmente haciendo referencias incluso en la interpelación que usted pueda hacer de los amores

en relación a algo que dije el treinta de enero del año dos mil trece también desde el treinta de enero hasta ahora ha habido tiempo para desamores

decirle que desde el treinta de enero yo he mantenido cinco reuniones con el señor rajoy y que

es por la que usted me demanda que es la del quince de septiembre no de junio bigarrenik

impulsar la reactivación y apoyar las oportunidades de generación de empleo

obrero español y lo sabe también el partido socialista de euskadi como con el gobierno español actual he planteado la necesidad de pactos de estado en este ámbito entre ellos el referido a la reactivación económica y la generación de empleo ni con el gobierno

ni con el gobierno español actual he encontrado eco a lo que es mi planteamiento de pacto de estado necesario

rajoy es más le he planteado la necesidad de mirar a europa y le he planteado mi preocupación

manifestadas también ante las autoridades europeas he insistido también ante rajoy en la necesidad de una nueva política económica europea de estímulo a la economía productiva real este es el planteamiento público que realicé en el global fórum de bilbao ante las altas autoridades europeas esta prioridad económica ha estado muy presente en mi agenda en todas la reuniones

el noventa por ciento de nuestro tejido económico las medidas que desde el instituto de crédito oficial se podrían plantear la ayuda a la internacionalización de la empresa

o la energía o la inversión e innovación como también el sector de bienes de consumo y el de distribución he manifestado siempre y reitero ahora que ambos gobiernos

en el entendimiento en este campo económico la crisis nos afecta a todos y las medidas a adoptar tendrán que ser necesariamente compartidas o tendrían que serlo sigo pensando hoy como entonces que debería haber campo para el entendimiento en el plano económico y también tengo que decir que los resultados

no se han materializado por parte del gobierno español por lo tanto insisto en lo de los desamores más allá de lo que son las formas correctas de relación

sigo defendiendo que es necesario trabajar por el diálogo el entendimiento y el acuerdo y no voy a dejar de creer en este escenario porque es mi obligación y mi responsabilidad como lehendakari

mi disposición va ha ser positiva y no voy a cerrar las puertas a acuerdos

la salida de la crisis con la mayor fortaleza posible y esta actitud no es de ingenuidad sino de perseverancia y de responsabilidad de hecho este fue el motivo por el que insistí

de avances prácticos en las cuestiones planteadas ya desde el treinta de enero del año pasado una reunión en la que planteé nuestras propuestas en los tres ejes prioritarios

crecimiento económico y empleo paz y convivencia avance en el autogobierno beraz moncloan irailaren hamabostean izandako bilera

une bakoitzean oraindik konpondu gabe zeuden gaien gainean la reunión celebrada el día quince de septiembre en la moncloa ha sido la quinta que hemos mantenido lo he dicho antes

una documentación detallada con las cuestiones pendientes y cuenta usted señor con la remitida a una pregunta formulada por escrito por una compañera de su grupo parlamentario recientemente y firmada en el día de ayer como respuesta por mi parte la particularidad de esta última reunión es que el día treinta y uno de diciembre

el límite para determinados acuerdos que se podrían alcanzar o deberán esperar a la siguiente legislatura y en este sentido en la reunión del día quince de septiembre

que a mi juicio deben ser abordadas con mayor urgencia dada su componente económica y presupuestaria y de entre todas las cuestiones planteadas particularmente estas últimas así

y esta es una de las materias urgentes e importantes pendientes de una negociación y un acuerdo que debería propiciarse antes del día treinta y uno de diciembre

las inversiones necesarias del estado en euskadi que deben ser recogidas en los presupuestos generales y en este sentido destaqué dos objetivos prioritarios el tren de alta velocidad

se encuentran comprometidas y que requieren del impulso y la decisión del gobierno español en relación al tren de alta velocidad sabe por lo que haya podido seguir en los medios de comunicación estos días qué es lo que pienso el propio presidente rajoy expresó este mismo año

hoy quiero señalar con absoluta claridad que el anteproyecto de presupuestos generales

el ministerio de fomento ha previsto solo doscientos millónes de inversión para el año dos mil quince y si estas dotaciones no se amplían con urgencia corremos

quiero recordar también que la unión europea declaró prioritario el eje ferroviario atlántico

en relación al aeropuerto de foronda el gobierno español ni ha contemplado la posibilidad de recuperar su apertura veinticuatro horas y lo que es más preocupante

yo sé que hay distintas informaciones y distintas publicaciones y yo me hago eco de ellas y yo sé que además se especula y bastante y usted sabe además por qué con que

con el presidente del gobierno y más conversaciones de las que se hacen públicas

que sin que se den informaciones de encuentros o de reuniones se habla de contactos secretos que obviamente o no han existido o

porque me parece que son las menos relevantes en qué fecha se ha reunido o ha conversado usted con el señor rajoy yo desde luego quedaría muy sorprendido

sin hablar con el presidente del gobierno de españa que el presidente del gobierno de españa a usted no le considera

con usted no quiere saber nada de temas que son importantes para españa y para el país vasco por lo tanto

el acento en lo accesorio sino pongamos el acento en lo fundamental y lo fundamental es saber si este

defiende su autogobierno si este gobierno hace algo y consigue resultados cuando le meten mano en la cartera porque le ponen un cupo que es el doble que el que estaba hasta ahora pactado en la comisión mixta del concierto es decir que el concierto hay que defender los órganos de encuentro y hay que defender la posición económica que el país vasco tiene que tener y sobre esto es sobre lo que queremos saber resultados lo que

es fundamental para el país vasco para su desarrollo económico y para el desarrollo del empleo es qué pasa con los recursos económicos que debieran de llegar vía presupuestos generales del estado para hacer una serie de cosas que yo he citado antes y que usted también las ha citado

cómo el grupo parlamentario del partido nacionalista vasco en cortes generales preguntaba como si fuese un logro hace unos días si para el dos mil veinte estarían hechas las conexiones del tren de alta velocidad como conformándose

escuché de la ministra de fomento decirle oiga si yo sigo siendo ministra estará muchísimo antes

en algunos de los proyectos políticos que son imprescindibles necesarios para este país

en esta misma semana y ante esto es a lo que usted tiene que responder usted tiene que responder nos dejamos reducir la infraestructura de un aeropuerto a menos de un tercio de lo que antes era y que además luego para intentar tapar todo eso

nos llevamos el dinero de los alaveses y de los alrededores allí y además nos cuesta a lo público un montón de cientos de miles de euros sobre eso hay que responder hay que responder sobre las dificultades los problemas que hay para desbloquear

pero que ha estado bloqueada durante un determinado tiempo y que no sé si está ya en el desbloqueo pero que sin embargo ese es un problema que nos tiene que afectar

para hacer políticas inversoras para hacer políticas de motivación de la economía y para hacer políticas en relación con el empleo y sobre esto

ya sé que usted tiene buenas intenciones porque como sale aquí y lo dice para qué voy a dudar yo de sus intenciones pero

entonces sobre todo esto usted lo único que me contesta es que tiene perplejidad de no sé qué tenga perplejidad de los problemas que sufre la economía vasca tenga perplejidad de la dificultad de las inversiones de la caída de las inversiones en los presupuestos generales del estado

por cómo evoluciona la economía y el empleo en el país vasco y cuál es la tasa de paro que tenemos esa es la perplejidad y sobre esto yo quiero concreciones

es decir nosotros no dejamos a nadie tirado en ese tipo de políticas nosotros estamos comprometidos como lo hemos demostrado

nosotros queremos a este país queremos a su ciudadanía queremos su autonomía queremos que salga de la crisis y nos mojamos nos manchamos tomamos partido como decía el poeta porque hay que tomar partido en ese tipo de cosas por lo tanto insistimos empujamos porque estamos comprometidos y estamos implicados en ello y lo mínimo que tendría que hacer usted porque es su obligación es su responsabilidad pero también sería una parte de la lealtad de usted hacia nosotros por los compromisos políticos que adquirimos
es que nos diera respuestas concretas y no se quedara un poquito en las nubes eskerrik asko prieto jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor prieto más allá de la perplejidad a la que me he referido en mi primera intervención y que usted pretende darle la vuelta a la tortilla en esta segunda intervención suya con su habilidad dialéctica de enredar todas las cuestiones usted

en junio de este año cuando son del treinta de enero del año pasado dos mil trece

para reivindicarle las supuestas defensas del autogobierno que el lehendakari tiene que hacer o las supuestas defensas de determinadas cuestiones que yo le he insistido que he hecho una y otra vez en las cinco reuniones que he estado reunido con el

que he planteado y reiterado al gobierno español en la reunión del día quince de septiembre

y tampoco le oculto que voy a perseverar hasta obtenerla tenemos tiempo para comprobar la voluntad de diálogo negociación y acuerdo un tiempo

porque el día treinta y uno de diciembre es la fecha para que todos estos compromisos estén recogidos de una manera u otra en los presupuestos generales del estado y que la legislatura del gobierno español

el propósito del gobierno vasco va a ser siempre mantener una relación fluida y constructiva pero eso no quiere decir más que una relación fluida y constructiva en lo que

yo no doy la batalla por pérdida creo que nuestro derecho y nuestra obligación es seguir insistiendo la confianza en el diálogo y la insistencia nos han dado resultados esta misma legislatura hemos obtenido logros importantes en el ámbito económico señor prieto

el acuerdo para flexibilizar la deuda en relación también con la flexibilización del objetivo del déficit el déficit en dos años los acuerdos en el ámbito de la construcción naval

o el último que va a permitir ampliar la tasa de reposición en educación y con ello poder ofrecer una mayor estabilidad al empleo público sobre la tasa de reposición

el quince de septiembre y le planteé fui yo quien le planteó elevar la tasa de reposición

se está debatiendo se está discutiendo esta confianza en el diálogo y en el acuerdo lo hemos mantenido siempre y hemos sido coherentes lo que no entiendo es que usted realice estos planteamientos en esta segunda intervención tan altisonantes nuevamente un acoso al lehendakari que me parece que es justo desde la labora de la oposición pero que usted siga y persista

por qué no fue usted tan exigente cuando durante toda una legislatura su partido gobernaba en euskadi y también gobernaba en españa qué le impidió acordar el cupo

pendiente de liquidación desde el año dos mil ocho qué le impidió poner en práctica lo que ahora tanto exige

el gobierno anterior con el apoyo del partido popular con el límite de déficit cuando fueron ustedes

a qué viene tanta defensa de las condiciones laborales de la función pública cuando aplicaron ustedes ustedes aplicaron a rajatabla las medidas de reducción de la retribución

usted insiste en reclamar al lehendakari más presión ante el gobierno español lo que resulta una paradoja viniendo de un miembro relevante del partido socialista de euskadi y del partido socialista obrero español que durante toda una legislatura no fue capaz de lograr por sí mismo lo que ahora exige a los demás yo le pido coherencia

tanto en materia energética puesto que euskadi tuvo unos años de producción

lo que hay que hacer es hacer una verdadera apuesta por un modelo energético renovable un modelo sostenible porque apuesta por la producción renovable descentralizada

argi gera dadin y me encanta que ustedes hagan una y otra vez tanto en comisión como

pero de las palabras a los hechos tenemos unas empresas una tecnología perfectamente preparada desde el punto de vista de energía eólica

siendo punteros ahora bien resulta que cuando queremos poner

dónde la ponemos porque no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo a ese respecto usted me dirá señor maeztu dónde lo vamos a poner a partir de ahora en qué montes en qué mares

lo dijo el lehendakari desde luego tecnología tenemos

empresas dispuestas pero claro hay que acordar y lo tenemos que acordar en esta cámara dónde lo hacemos en qué ha quedado por tanto su apuesta por las energías renovables las que de verdad son rentables porque claro no me hable usted todavía de energías marinas porque aún no son rentables y tenemos alguna instalación no me hable de las

a día de hoy necesitamos la energía eólica como energía rentable dónde señor maeztu si somos capaces de ponernos de acuerdo desde luego el gobierno

en la comisión pero vamos a sentarnos y vamos a de verdad pasar de esas palabras a los hechos y a decidir dónde

y en qué formas porque hasta ahora desde luego ustedes palabrassí pero hechos no hemos visto muchas gracias eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

lehendakari antes o después a todo el mundo le puede ocurrir que en un momento dado el temperamento
le juegue una mala pasada a cualquiera le puede ocurrir que

pero todo el mundo no alcanza las más altas responsabilidades de un gobierno ni cualquiera llega a las más altas magistraturas de una institución

el incidente del uno de octubre en el que usted espetó a unos manifestantes con clara

con lo que parece su talante de hombre no dado al exabrupto ni al trazo grueso por eso usted comprenderá

es necesario preguntarle a ver qué criterio tiene sobre el derecho de huelga en manifestación pero le diré una cosa más aunque usted no responda a nuestra pregunta nos daremos por satisfecho si usted utiliza este trámite para pedir disculpas por aquel incidente lamentable

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor itxaso creo y respeto el derecho de huelga y de manifestación lo creo y lo respeto y como también me gustaría se hiciera un ejercicio de interpretación cabal

o expresar atendiendo al contexto y siempre que lo hubiera hecho siempre que lo hubiera hecho sin faltar al respeto a nadie cosa que siempre he intentado hacer

infinidad y siempre he mostrado respeto paciencia y reconocimiento al derecho de expresión y manifestación en situaciones muy comprometidas personales que las he sufrido se lo aseguro señor itxaso y en relación a lo que usted demanda

me pregunto y le pregunto también cree usted que yo estoy satisfecho con la imagen que se reflejó dando pie a interpretaciones variadas sin atender al contexto

la más adecuada lo reconozco pero insisto creo en el derecho de huelga y creo en el derecho de manifestación eskerrik asko eskerrik asko

no tengo por qué dudar lehendakari de que esa sea su verdadera vocación sin embargo el suceso y tal como fue recogido deja para la historia un incidente
del cual usted podía ver purificado esa situación con una expresión humilde como ha pedido anteriormente a nuestro grupo y también dentro de esa prudencia eso habría agrandado su persona y habría humanizado la institución que representa

y la respuesta la respuesta que es evidente no se corresponde con el suceso el suceso queda para la historia aún tiene una segunda oportunidad señor lehendakari

y eso le va a reconciliar de alguna manera desde luego con el grupo socialista quedaría por zanjado esta cuestión en adelante y en segundo lugar con las personas que legítimamente llevan adelante esas acciones reivindicativas porque entienden que la defensa de sus derechos requiere

que yo pudiera estar satisfecho con la imagen que se pudo reflejar

y lo que no le he dicho es que también yo me lo pregunto y yo me pregunto si estoy satisfecho no estoy satisfecho y si en alguna medida por interpretaciones variadas que se pudieron dar

encontronazo que usted ha mencionado así en su interpretación he de pedir disculpas lo hago sin ningún problema porque insisto en lo que ha sido la pregunta sustancial

creo en el derecho de huelga y creo en el derecho de manifestación

incluso un esfuerzo reconocido por mí varias veces

por solidaridad con las miles de personas que no tienen la suerte de tener un empleo fijo

ni alto ni bajo porque están en paro y

de mirar a nuestro alrededor para reconocer y para valorar lo que tenemos

el empleo público tiene mejores condiciones laborales que en euskadi quizás esta es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días

desde la conciencia y reconocimiento de que pueda haber interpretaciones fuera de contexto y que puedan dar lugar a una imagen del lehendakari que no se corresponde con la realidad ni con lo que con el máximo respeto quise hacer en aquel momento si hay interpretaciones

sí gracias presidenta lehendakari la pregunta es breve y

vasco ha presentado el programa hitzeman programa que al parecer usted mismo

de españa yo le quiero preguntar si a través de este plan o a través de

si el gobierno vasco va a defender la impunidad de los presos de eta

la dignidad de la sociedad vasca democrática y memoria justicia verdad y reparación para las víctimas del terrorismo gracias

señor maneiro también la respuesta breve ante la pregunta breve porque se la ofrecí incluso en el encuentro que mantuvimos personalmente el otro día en lehendakaritza

ni defiende ni va a defender la impunidad el gobierno se ha comprometido con la clarificación del pasado con la memoria crítica de lo ocurrido y los derechos de verdad

consejo de gobierno el veintiséis de noviembre del año pasado eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias lehendakari efectivamente usted mismo me dijo en aquella reunión que el gobierno no pretendía defender la impunidad de los presos de eta pero

en público en abierto y en este pleno y por eso he querido mantener esta pregunta

el gobierno ha planteado un plan de reinserción aunque no tiene competencias para ello y también sabemos que el gobierno vasco quiere cambiar la política penitenciaria

se reinserten esto lo sabemos yo le pido que diga públicamente que no puede haber ningún tipo de impunidad y que va a trabajar todos los días del año para ello ahora y en el futuro y yo le pido que defienda a las víctimas del terrorismo la justicia la memoria la verdad

y en general la dignidad de la sociedad vasca pero yo le pido que esto lo diga en la tribuna

y que permanentemente recuerde a la sociedad que se compromete en la consecución de esa serie de objetivos yo quiero que usted diga públicamente que los presos de eta deben cumplir sus penas usted me lo dijo en la reunión que efectivamente piensa así quiero que usted pueda decirlo aquí también que los presos de eta deben cumplir sus penas y que recuerde públicamente y acepte

para que puedan acceder a beneficios penitenciarios que es exactamente lo que dice la ley me gustaría que usted también lo dijera

para que los presos de eta puedan acceder a beneficios penitenciarios porque en este plan se habla de explorar el potencial que la legalidad ofrece pero yo le quiero recordar qué es exactamente lo que dice la ley y lo que dice la ley es

que los presos de eta deben cumplir cuatro requisitos que están perfectamente establecidos para poder acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario

romper con la banda pedir perdón pedir perdón públicamente

porque los crímenes cometidos son públicos y por lo tanto el perdón o la petición de perdón debe ser también pública reconocer el daño

a las responsabilidades que correspondan y colaborar con la justicia

pendientes de resolución a mí me gustaría tener un lehendakari que dijera todas estas cosas más allá de que en otros asuntos

y democráticos los pudiera decir un lehendakari que pudiera ser considerado lehendakari de los ciudadanos vascos yo espero por lo tanto

de la democracia con la defensa de la ley y que garantice que no pueda haber

y que va a defender siempre y en todo lugar a las víctimas del terrorismo y a la sociedad democrática gracias eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

ni defiende ni va a defender la impunidad memoria verdad justicia reparación conceptos que

unas cuantas veces no solamente conoce usted el plan de paz y convivencia sabe también que hemos encargado un informe sobre la situación procesal de todos los asesinatos perpetrados desde mil novecientos sesenta cuyo resultado conoceremos este mismo año usted sabe

está establecida la división de poderes los gobiernos no deciden sobre el cumplimiento de las condenas esta competencia corresponde al poder judicial lo que sí está en manos de los gobiernos es promover los procesos de reinserción y de resocialización y usted lo sabe por lo tanto mi pregunta es

solo se me ocurre una respuesta usted pretende asociar reinserción con impunidad esto es grave esto es lo contrario a la constitución que usted dice respetar pero al parecer solo cuando le conviene señor maneiro

se sitúa en el espíritu y contenido del principio de reinserción que la constitución española consagra el programa hitzeman cumple con el espíritu

de la ley es una vía de apoyo a los procesos legales de reinserción no es una respuesta excepcional

que son aceptadas por las instituciones penitenciarias hitzeman es una vía legal y es una vía oportuna conveniente y necesaria

usa y abusa del recurso a la ley hasta el punto de retorcerla y distorsionarla sin ningún rubor y con un descarado interés partidista sí señor maneiro porque mire ha hecho referencia usted

que lea más las leyes y manipule menos lea más las leyes y manipule menos lea la constitución el artículo veinticinco punto dos

lea el artículo doce de la directiva del parlamento europeo y del consejo sobre víctimas

lea el artículo diez del estatuto de autonomía sobre las competencias en materia de reinserción lea el artículo doce de la ley orgánica general penitenciaria en relación con el acercamiento de presos lea el artículo cuatro del reglamento penitenciario en el que vienen definidos los derechos que corresponden a las personas presas lea el artículo cien y el artículo cien punto dos

o el artículo ciento cuatro sobre presos enfermos lea porque todo esto forma parte de la ley que usted invoca solo a conveniencia señor maneiro

asuma la ley y manipule menos eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera

sí señora consejera pero procuremos hacer esta interlocución eficiente eficiente para la sociedad que la está esperando

representantes de los trabajadores que también lo hacen nos gustaría avanzar avanzar en qué tipo de propuesta tiene usted tenga usted en cuenta que en la anterior legislatura

también había tasa de reposición según ha dicho el señor erkoreka en dos mil once pero yo le voy a hacer una propuesta señora uriarte en dos mil once

y no prevaricamos negociamos por tanto señora uriarte

supere esa cifra porque su estado es de mayor necesidad nosotros nos encontramos con una interinidad del veintisiete por ciento y la redujimos

pudimos descender en diez por ciento con dos mil quinientos en tres ofertas públicas de empleo a usted le quedan dos años supuestamente para concluir la legislatura

el treinta por ciento y si sumamos los funcionarios provisionales usted tiene una provisionalidad del cuarenta por ciento desde luego el estado de necesidad está acreditado es grave por lo tanto vaya usted negocie

que ha negociado otra serie de cosas vaya usted a la administración general del estado y negocie con los ministerios competentes y negocie para que a usted le permitan sacar una oferta pública de empleo en el entorno de esa cifra sobre qué fundamentos primer fundamento estado de necesidad un estado de necesidad que en la comparativa sale en cabeza usted es la comunidad autónoma que más interinos tiene y teniendo en cuenta que lo deseable sería alcanzar un ocho por ciento y que también un gobierno tiene obligación de mantener un empleo público estable sobre ese estado de necesidad y sobre su propio autogobierno negocie con el gobierno y logre logre el efecto consiga tener una oferta pública de empleo amplia y amplia no es quinientos plazas

usted tiene que conseguir superar aquella de dos mil once aquella

señora celaá yo creo que por negociación que no quede creo que en el tiempo que llevamos en este gobierno

y realmente hemos tenido resultados y los hemos traído aquí aunque algunos a pesar de todo no les terminen de gustar

la pnl aprobada en abril habla efectivamente de convocar opes dentro del marco normativo vigente

afrontar una ope supone un esfuerzo importante quien se prepare para estas pruebas debe contar con todas las garantías de que el proceso será valido en la actualidad la tasa de reposición

y según lo anunciado por el gobierno de españa el año que viene ese porcentaje subirá al cincuenta

desde luego mi departamento va a aprovechar hasta la última décima de ese porcentaje vamos a ofertar todas las plazas que nos permita la norma aunque le aseguro que me encantaría que la situación fuera otra

en este caso para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes esperamos que antes de que finalice el año en diciembre realicemos la primera de las convocatorias en base al límite del diez por ciento actua l y cuando finalice el dos mil catorce y sepamos exactamente el número

anunciaremos en enero la segunda convocatoria las pruebas tendrán lugar el próximo mes de julio

lo que tenemos que conseguir por una parte y creo que es la parte primordial es que nuestros baserritarras nuestros ganaderos nuestros arrantzales perciban

y nuestro trabajo como gobierno es conseguir que ese producto se comercialice tanto

y como ha dicho usted tenemos dos acuerdos firmados tanto con uvesco como con eroski en canales cortos de comercialización o en pequeñas tiendas en pequeños comercios esa es nuestra obligación y por otra parte conoce usted sin duda que la venta a pérdidas

tipificada y está perfectamente regulada en cuanto que no se puede realizar y sobre todo está encaminada a los pequeños comercios pero no confundamos creo que en este caso
tenemos que centrarnos en lo que nuestros baserritarras insisto arrantzales y ganaderos perciben por su producción eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

harira comentábamos por una parte los convenios no son suficientes pero sí necesarios y han permitido que en diez meses la puesta en marcha de una serie de actividades y de una serie o de la puesta en marcha de los acuerdos

la patata de álava con eusko label carne de vacuno se haya multiplicado y haya crecido en esas estanterías no es suficiente por supuesto que no también estamos trabajando no solo supermercados sino canales cortos y la puesta en valor de nuestros productos pero

el problema es que la leche también hay que trabajar en internacionalizarla como el resto de productos y esa es obligación también del gobierno conseguir que se produzca

pero también se consiga internacionalizar y esa también es tarea del gobierno no podemos consumir y no debemos consumir todo lo que producimos y tengamos en cuenta otra cosa sé que no es su modelo económico me lo ha dicho en muchas ocasiones pero vivimos no solo en un país sino en una unión europea en la que el libre comercio existe donde existen unas garantías

donde los precios se establecen de acuerdo con una serie de políticas y donde ningún gobierno puede intervenir a no ser que repito se vendan a pérdidas por tanto vamos a trabajar por que esos productos sean consumidos en euskadi

y todos los productores tengan un precio justo para eso que están produciendo porque no solo es el caso de la leche todos los productos en euskadi y no solo del sector primario requieren y tienen unos costes superiores eso no evita que sean comercializados e internacionalizados el sector primario también tenemos que conseguir que entre en esa cadena eskerrik asko

kontutan hartzen ez dituena hori da daukaguna se trata de una medida sistemática generalizada adoptada a destiempo y sin tener en cuenta las diferentes realidades un café para todos que una vez más lejos de adaptarse a la realidad

supone un despropósito por varios motivos la principal consecuencia negativa de este canon bibliotecario es el efecto que puede tener en la disminución de la cantidad destinada a la compra de fondos de las bibliotecas públicas es decir se corre el riesgo de que estas cada vez se hagan con un menor número de novedades y reposiciones

por ello el gobierno vasco viendo que no dispone de margen para negarse a la aplicación de la norma

medidas todas ellas orientadas a reforzar la financiación pública a los fondos de las bibliotecas municipales con el objeto de paliar dentro del ámbito de sus competencias

en primer lugar un mayor compromiso de cofinanciación por parte del gobierno vasco para la compra de libros físicos en papel con el correspondiente alivio para las arcas municipales esta medida supone una flexibilización del compromiso de cofinanciación derivado de las ayudas que presta el gobierno para la compra de libros en papel

la misma cantidad que la sufragada por el gobierno vasco la realidad es que se asumía al cincuenta por ciento por ambas partes nuestra intención

siendo mayor el porcentaje aportado por el gobierno vasco que el aportado por los municipios

en segundo lugar se prevé la aportación de una cantidad adicional

y en tercer lugar la integración de las bibliotecas municipales de donostia san sebastián bilbao y santurtzi en la red de lectura pública de euskadi

la integración de estas tres importantes bibliotecas es una asignatura pendiente

esta acción conllevará la financiación por parte del gobierno vasco de la infraestructura informática que soportan dichos servicios municipales lo que redundará en la liberación de partidas

a través de dichas medidas se pretende reforzar la política de compra de fondos y minimizar el impacto de la nueva normativa

zentzugabekeria galanta dela eta arrazoi hauengatik en primer lugar supone una incoherencia en la responsabilidad del pago

la repercusión del pago en los organismos titulares de las bibliotecas reducirá el presupuesto de las mismas ello puede conllevar dificultades para el correcto cumplimiento de sus actividades educativas culturales y sociales pero por otra parte sería también discutible el pago por obras autorizadas y por aquellas que no son del dominio público

en segundo lugar existe una dificultad real del cálculo de las tasas

si ha sido adquirida para prestamo cuántos prestatarios reales ha servido la biblioteca

a día de hoy los sistemas de gestión bibliotecaria no están preparados para este nivel de detalle por lo que antes de pagar las bibliotecas necesitan adaptar sus sistemas informáticos

la aplicación misma de la ley y en tercer lugar la inequidad de la recaudación establecida

que no representan si tenemos en cuenta el número de altas que no de compras que recoge la estadística de bibliotecas dos mil doce del ine el pago global que debería hacerse por los libros incorporados a las bibliotecas públicas y centrales

con lo que habría que sumar otros veintitrés mil euros por los documentos sonoros y otros sesenta y siete mil euros por los audiovisuales

esta cantidad no tiene en cuenta si las obras tienen derechos de autor si han sido compradas para prestamo o sin tan siquiera han sido compradas ya que pueden haber sido donadas

y películas lo cierto es que el sistema aprobado tampoco garantiza que con estas cuantías

zurea da hitza muchas gracias señora presidenta

diez de septiembre compareció en la comisión de educación de este parlamento

de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales de álava

les escuchamos tuvimos la oportunidad de escucharles aquel día conocimos la situación que sufren

hijos en las escuelas sus denuncias y también conocimos sus propuestas nos trasladaron propuestas para garantizar una educación de calidad

ese alumnado que necesita una atención específica por parte de su departamento obtenga de verdad una respuesta

una atención especial y una atención específica que es lo que reclamaban esas familias nuestro sistema educativo como usted bien sabe

a dichas necesidades a través de tres modelos el modelo de la integración aquel

aula con el resto del alumnado de una manera natural y ordinaria pero requiere

para atender sus necesidades específicas el de las aulas estables en el que de un uso exclusivo de este

de una manera más permanente necesita de un profesorado especializado y en tercer lugar

modelo llamado centro específico en este caso en la comunidad autónoma vasca solo disponemos de uno un centro específico de atención para la educación especial el

encontramos en este colectivo y como usted además conoce bien realidades de muy diversa índole

autismo diferentes grados de discapacidad de afectación motora

problemas de desarrollo cognitivo etcétera problemas diversos que requieren atenciones diversas atención específica a cada uno de los problemas que requieren los alumnos escuchamos las denuncias de las familias denunciaron

de fisioterapia que no se corresponde con una mejoría en el desarrollo de sus hijos del alumno puro criterio economicista nos decían

la asignación se realiza de una manera global la asignación de logopedas de fisioterapias de pedagogos terapéuticos se realiza todo de una manera global sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada alumno sin saber

se encuentran alumnos con necesidades especialmente graves o no

de las familias que cae también la asignación de horas como le decía en logopedia

en pedagogía terapéutica que falta información y los padres y madres denunciaban falta de información falta de comunicación entre los docentes entre los docentes

que se restringe la participación de las familias que no se da cuenta de las decisiones educativas y de las estrategias a seguir que no se da cuenta a las familias

en relación con la educación de sus hijos ni tienen voz

denuncian una excesiva rotación en el personal fruto de los recortes que por supuesto manifestaban que

de educadores en el mismo día y por supuesto cambio

de personas encargadas de la educación de sus hijos a lo largo de

de personal que dificulta mucho más la comunicación de los docentes de los educadores con las familias y de los propios educadores entre sí para seguir de manera continuada y de cerca el progreso de sus hijos los diferentes responsables del departamento de educación a lo largo de estos años

de integrar en el sistema público al alumno al alumnado con necesidades especiales algo que todos hemos compartido aquí

en pleno y en comisión para apoyar algo que siempre hemos defendido en los últimos años inclusión integración y además

son valores que siempre hemos decidido poner entre los objetivos fundamentales de la acción educativa referida a los alumnos con necesidades especiales sin embargo de un tiempo a esta parte no es la primera vez que ocurre la denuncia de estas familias

son menos los recursos empleados por el gobierno vasco para el apoyo de estos alumnos y alumnas esa es la percepción de las familias porque ven como el apoyo de horas el apoyo de profesores se suprimen plazas

de carácter especial y esa percepción está ya llegando a la mayor parte de las familias que agrupan a este colectivo por eso

nos diga cuales van a ser en este caso las medidas de su departamento para dar respuesta a estas reclamaciones le pedimos que la integración sea un objetivo primordial en la acción de su gobierno la integración y que se dote además de los medios humanos y materiales necesarios

que igualar las dotaciones humanas y materiales sea igualar al alza no que se diga

en álava están por delante en la atención al alumnado con necesidades especiales

álava no puede retroceder en lo que han sido hasta ahora la prestación y la atención a los alumnos

si álava está por delante lo que tiene que hacer su departamento es lograr

y gipuzkoa se igualen al alza en la prestación de esa atención álava no puede retroceder en este igualar al alza señora consejera que se tengan en cuenta las particularidades de cada alumno antes de tomar decisiones sobre su escolarización y asignación de recursos

de necesidades concretas de necesidades particulares de cada uno de los alumnos que además de tener en cuenta lo que antes le he detallado en relación con los profesionales de fisioterapia logopedia pedagogía terapéutica y efectivamente sus necesidades que se les tenga en cuenta además

de una manera más decisiva la opinión de esos profesionales a la hora de decidir estrategias en relación con la educación y la atención de sus hijos mejor información como le decía

información periódica con las familias interlocución periódica con las familias continuidad en el personal la rotación exagerada

de ese servicio y desde luego que se implementen medidas urgentes que permitan porque efectivamente era una preocupación enorme de esas familias que se implementen medidas por parte de su departamento

a aquellos jóvenes que están a punto de finalizar la educación obligatoria y que efectivamente les permita tener más opciones opciones apropiadas de educación y desarrollo personal una vez que concluyen la educación obligatoria como usted sabe se encuentran con dificultades añadidas me va a permitir

pero los jóvenes con necesidades especiales se encuentran con problemas añadidos de desarrollo

al término de la educación obligatoria nosotros creemos que es hora dar una respuesta y que su gobierno tiene que dar una respuesta clara y concisa

ikasle horiek baztertuta eta kalitatezko hezkuntzaren beharrean egoten dira maiz entre las acciones desarrolladas cabe destacar las siguientes

a través del personal especializado necesario para ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales dotación de recursos humanos en centros públicos profesorado especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje

etcétera dotación de material didáctico y mobiliario específico

sensorial o motriz y dotación de personal especializado itinerante fisioterapeutas terapeutas ocupacionales equipo de orientación y asesorías en berritzegunes entre otros

se otorga la necesaria financiación a través de conciertos educativos para aulas de educación especial en la red concertada aulas de apoyo en educación infantil primaria y secundaria

asimismo se ofrecen subvenciones a centros concertados que requieren contratar personal especialista de apoyo educativo

también se desarrollan centros de apoyo a los centros educativos ordinarios

domiciliaria y terapéutico educativa para el alumnado que

centros para la inclusión del alumnado con discapacidad visual y equipos para la atención del alumnado con sordera

y por último se han suscrito diversos convenios de colaboración con otras entidades se han firmado sendos convenios con osakidetza para el asesoramiento en la inclusión educativa del alumnado con discapacidad motora

también tenemos un convenio con la federación vasca de asociaciones a favor de la discapacidad intelectual fevas y por último otorgamos también una subvención a la asociación prosordos gregorio ybarra y a foaps

quisiera resaltar especialmente que la respuesta al alumnado con enfermedad se puede realizar desde el ámbito hospitalario desde el contexto domiciliario y desde el terapéutico educativo estos tres ámbitos de atención hospitalaria domiciliaria

dan respuesta en nuestra comunidad de forma global a través de un servicio de apoyo con sede en cada territorio en araba bizkaia y gipuzkoa como servicio de apoyo que tienen una visión panorámica

no hay otra comunidad en el estado español que disponga de esta estructura global

como es el caso de álava donde se estaba ofreciendo un servicio por encima de lo establecido e incluso por encima de las necesidades reales del alumnado como es de imaginar hemos tenido que

por ello se han mantenido diversas reuniones de trabajo con responsables del área de innovación educativa de educación especial traumatología infantil y rehabilitación del hospital universitario de araba

como consecuencia de estas reuniones se han establecido mecanismos de coordinación y de control para el curso dos mil catorce dos mil quince con el objetivo final de regularizar la situación y ofrecer las mismas garantías y posibilidades a todo el alumnado con necesidades educativas especiales

además de que el objetivo de que los recursos asignados en este ámbito debe de ser garantizar que estos alumnos y alumnas puedan llevar a cabo sus estudios con la mayor normalidad posible son recursos para ayudarles a estudiar y a ese campo se debe de acotar la función de este servicio

la apuesta por la inclusión y la necesaria racionalización y equidad en la distribución de los recursos públicos eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señora consejera la verdad es que me deja todavía mucho más preocupado después de su intervención y por supuesto

una moción para defender aquí las reclamaciones de las familias porque usted está obligada a atender de una manera adecuada

a soltar responsabilidades es que la responsabilidad que nosotros le reclamamos aquí es de su departamento del educativo

subvenciones a asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad

la asociación con discapacidad visual oiga que yo le estoy diciendo que usted tiene la obligación ya me imagino que hacen cosas claro es que claro que llevamos haciendo cosas en relación con la educación con el alumnado que tiene necesidades especiales

está empezando a hacer menos que lo que se venía haciendo que usted no esta respondiendo a las necesidades hoy de esos alumnos claro que están haciendo cosas es que usted está obligada a hacerlo es que nuestro sistema educativo le obliga a usted por ley a ofrecer una enseñanza normalizada integradora y de calidad a los alumnos con necesidades educativas especiales y para ello debe responder

su responsabilidad su responsabilidad para con las familias su responsabilidad en la falta de información aportando más información

interlocución entre los docentes entre los docentes y las direcciones de los centros y de los centros con las familias

su responsabilidad y su obligación por supuesto que su obligación es la de garantizar que no se retiren profesionales pedagogos

o fisioterapeutas claro que esa es su responsabilidad la de responder ante los recortes esa es su responsabilidad porque estamos aquí hablando de prioridades en su departamento parece que tienen recursos para otras cosas pero oiga le traemos aquí y hacemos de altavoz de las familias para traerle aquí casos concretos en los que su departamento está recortando

con la atención a los más débiles del sistema se está recortando en la atención a los más débiles del sistema y eso es lo que hoy venimos a reprocharle a usted y a recabar

usted está diciendo que en álava se estaba atendiendo en exceso a los niños con necesidades especiales

como ejemplo aquellos lugares donde se hacen las cosas bien usted tiene la responsabilidad de que en bizkaia y gipuzkoa

a esas familias y a sus hijos y a sus hijas usted cómo puede venir aquí a decir que para igualar en la atención lo que vamos a hacer es recortar la atención de los alaveses

en esta cámara nosotros venimos a reclamar más información venimos a reclamarle más recursos venimos a reclamarle que se empeñe usted de manera personal

las asociaciones que ya trabajan en ese campo de la discapacidad no su departamento

o están tratando de resolver el asunto con a ver si lo soltamos en los centros integrados eso no es dar respuesta

dar la respuesta que las familias esperaban de un gobierno que se decía comprometido con la integración y con la inclusión están haciendo ustedes todo lo contrario se necesita información veraz pero es que se necesita además que se dé una respuesta

no aceptan a más alumnos usted tiene que dar una respuesta y no me ha contestado en relación con

las medidas que toma su departamento para dar una respuesta a los alumnos con necesidades especiales que terminan la etapa obligatoria tiene que darles una respuesta tenemos que favorecer su desarrollo personal su responsabilidad

resolver el asunto mientras están ahí a ver dónde los colocamos a ver dónde los dejamos y luego les damos la patada al terminar la etapa obligatoria usted tiene una responsabilidad para con las familias que en este momento tienen a niños niñas

con necesidades especiales en nuestro sistema educativo nuestro sistema educativo es el que tiene que dar una respuesta y además lo tiene que hacer desde el servicio público no soltando responsabilidades
en otros agentes lo tiene que hacer desde el servicio público nada más y muchas gracias eskerrik asko

besterik gabe geratuko nosotros queremos analizar y analizamos caso a caso y queremos ofrecer a cada alumno y alumna con necesidades especiales la respuesta que cada momento requiere una solución adaptada a su caso específico siempre con el objetivo de que los recursos y profesionales específicos

evitando las situaciones de segregación así mismo la colaboración que este departamento tiene con las familias de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales

se pone de manifiesto en las distintas comisiones establecidas para el seguimiento del alumnado con discapacidad intelectual trastornos del desarrollo visual y auditiva también en la disposición que tiene este departamento en el enriquecimiento de estas comisiones incluso en la creación de nuevas

educativas especiales deben colaborar todos los agentes sociales

los objetivos educativos establecidos con carácter general ese es nuestro objetivo y en ningún caso

la ayuda a ningún niño que la necesitara al menos que a mí me conste

una situación que no era del todo regular por supuesto consideramos que los presupuestos

procedido a revisar corregir una situación irregular que era lo que estábamos comentando

y alumnas con necesidades especiales se ha aumentado la partida presupuestaria con respecto al año anterior

también se han celebrado numerosas reuniones por lo tanto y con las familias se mantiene el contacto con ellas y en cuanto

al dar la información que se nos solicita yo creo que a pesar incluso el trabajo ingente que nos ha supuesto por no disponer de una aplicación informática

se ha dado y se ha dado y eso nos va a permitir dar una respuesta mucho más adecuada en la próxima en próximas solicitudes yo creo que
estamos abiertos damos respuesta y tendremos que seguir ajustándonos todos eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

su trabajo no sin dificultades de hecho la prueba se paró dos horas y pico después de acabar estaban muertos nosotros

nosotros ya sabíamos desde el principio que los bueyes estaban dopados expone juan miguel ranero presidente de la federación vizcaína de herri kirolak

el dopaje y la trampa siempre ha estado presente recuerdo que hace más de veinte años planteamos

y la idea no hizo demasiada gracia a los que estaban metidos en ese mundillo dice un especialista en la lucha contra el dopaje hay quien por dinero simplemente por el orgullo de ganar es capaz de cruzar todos los límites es alucinante

en estas pruebas tenemos una ley señora consejera tenemos una ley desde hace dos años

lo referido al dopaje también en los animales ha sido absolutamente decepcionarte las recientes noticias y quien

es práctica habitual en el deporte rural en la modalidad de idi probak en esa práctica con apuestas en la que se ha comprobado a través de las informaciones

que el presunto fraude puede tener una triple dimensión además está la deportiva la ecológica en relación con la protección de los animales y está la económica

sin embargo dicha ley aborda la problemática del dopaje en los deportes con animales únicamente desde la perspectiva de la limpieza de la competición deportiva

en este sentido las comunidades autónomas tienen dictadas sus propias normas en esta materia al amparo de sus competencias en materia de protección de animales de hecho

de protección de animales establece la prohibición de suministrar a los animales alcohol drogas o fármacos o practicarles cualquier manipulación artificial

aun cuando sea para aumentar el rendimiento de una competición posteriormente en el desarrollo de la ley

en aplicación de dicho decreto corresponde a los órganos forales

dichos órganos deben remitir posteriormente a la agencia vasca antidopaje los resultados de los análisis realizados y es la federación vasca de herri kirolak

la práctica en la aplicación de su normativa disciplinaria sanciona los casos de dopaje que se detesten

podrá usted decir que no es lo mismo pero es lo mismo igual que hablaríamos de

contra el dopaje para proteger al deportista y en este caso para proteger también a los animales es decir

estos dos años de vigencia ha habido un incumplimiento

esto se sabe esto es práctica habitual no es la primera vez que pasa lo de erandio es práctica habitual lo hemos oído

a miembros que participan desde luego en la organización en estas cuestiones y además ahí están jueces hay veterinarios es decir y la ley además habla de la responsabilidad del personal del entorno y de los animales que participan en competiciones deportivas

el ámbito de aplicación del régimen disciplinario régimen disciplinario qué van a hacer en relación con el régimen disciplinario con los responsables de todo este desaguisado ámbito de aplicación del régimen disciplinario en relación

sanciones a médicos médicas los deportistas y veterinarios en el caso y hay sanciones específicas sí que queremos nosotros conocer qué se va a hacer para atajar definitivamente esta cuestión hemos oído que ahora a raíz del escándalo la diputación de

ultima un decálogo qué es un decálogo si tenemos una ley

de deportes y la responsable de dopaje en el deporte porque la ley es suya es decir dos años después de la ley este escándalo pero que ya es conocido por lo que hemos

señora uriarte qué va a hacer usted para atajar este escándalo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea zurea da hitza

en dos mil doce se aprobó una ley contra el dopaje en el deporte como usted

únicamente desde el punto de vista de la limpieza de la competición no de la protección de animales edozein kasutan

ez dakigu zenbat gehiago ordaindu beharko dugun horregatik porque señora consejera esta convocatoria está plagada de irregularidades de principio hasta el fin

pero a e i te be le está costando mucho dinero primero en abogados porque la dirección se ha empeñado en no escuchar a nadie y le va a costar más

por quienes van a ser despedidos esta es solo una de las consecuencias la otra es que la radio pública vasca y sus trabajadores están sufriendo un conflicto desconocido hasta ahora

y no se descartan que sigan las protestas que haya nuevas protestas por eso señora consejera le preguntamos que usted que es quien ha propuesto a la actual directora

a la decisión de la dirección de e i te be de eliminar puestos de trabajo en la radio pública vasca eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

por ello este gobierno y la dirección de e i te be y les recuerdo que también la mayoría

del que usted forma parte entienden respetan y apoyan este proceso y lo hacen precisamente porque comprenden que el alcance del empleo público ofertado mediante dicha convocatoria se ha realizado atendiendo a las necesidades organizativas previstas así como a las posibilidades presupuestarias existentes el consejo de administración

al estar constituido por representantes de la dirección por representantes de los sindicatos con representación en la empresa y por

y me gustaría subrayar que todas las decisiones que ha adoptado dicho tribunal hasta la fecha han sido adoptadas por unanimidad incluida la aprobación de las bases de la convocatoria pública de empleo la gestión del proceso y la resolución de las reclamaciones unzalu jauna lan enplegu eskaintza publikoaren prozesuak aurrera jarraitzen du

que hablamos en este pleno de control sobre ope las tres anteriores a preguntas de mis compañeras blanca roncal isabel celaá y gloria sánchez tanto usted como el señor darpón y el señor erkoreka han

utilizando el tiempo verbal de futuro haremos aprobaremos convocaremos etcétera pero precisamente la única ope que está aprobada convocada y como usted y yo hemos dicho a punto de finalizar es la que destruye empleo público la única

para contratar a cuarenta y nueve y esta es la única que está a punto

el resto futuro hay más

nos ha dicho que va a convocar un concurso de traslados y que también va a hacer una ope para quienes para los indefinidos por sentencia

indefinidas que van a ser expulsadas que van a ser despedidas de radio euskadi son también indefinidos por sentencia que diferente forma de actuar

porque los datos son esos setenta y nueve trabajadores y cuarenta y nueve en la ope convocada

en su primera intervención a esta pregunta han hablado de la seguridad jurídica incluso la han puesto como excusa para la demora en las

la más judicializada la que más recursos tiene que es la ope de radio euskadi ni han tenido ni la más mínima precaución han tirado sin tener ninguna seguridad

conseguir una plaza en esta ope y los están lanzando a la más absoluta inseguridad mire usted señora consejera

lo único que está hoy patente es que en el consejo de administración con su apoyo del gobierno vasco con el apoyo del pnv y con el apoyo eh bildu va a

una ope que destruye treinta empleos públicos que destruye treinta empleos de la radio

en este punto señor unzalu hay tres aspectos que son bien claros primero la aprobación

de la ope segundo la seguridad jurídica de la misma y tercero que corresponde a una regularización de situaciones irregulares de empleo

en todo caso ustedes saben que las reclamaciones presentadas ante el tribunal evaluador que es la máxima instancia que examina el correcto desarrollo de las bases y el proceso han sido resueltas con decisión aprobada con unanimidad

solicitado porque es imposible conocer dicha información a día de hoy

litigiosidad judicial que pudiera devenir en la fase final del proceso

una vez finalizado el proceso y adjudicadas las plazas pudiera devenir de posibles desacuerdos por parte de aquellas personas en situación laboral indefinida no fija que no consigan una de las plazas fijas como usted comprenderá no es que le neguemos la información sino que nos resulta imposible responder con rigor sobre hechos y evidencias que se van a

la verdad es que oyéndole he tenido la sensación de que estaba en misa oyendo un pasaje del apocalipsis de san juan en vez de en el parlamento vasco pero bueno

me ha parecido interesante efectivamente el consejo de gobierno aprobó el pasado siete de octubre la aprobación de los límites máximos de efectivos

reafirmando señora ubera su compromiso por mantener la plantilla estructural plantea usted que la plantilla

contextualizar entre los años dos mil cuatro y dos mil catorce

personas lo que demuestra la sensibilidad de los diferentes gobiernos para adecuar la plantilla estructural de osakidetza a sus necesidades

si conoce alguna empresa en euskadi que ha crecido más que esta me lo diga en este sentido cabe señalar que en ese periodo se han creado mil doscientos ochenta y seis puestos de médicos mil doscientos setenta y seis puestos de enfermería trescientos ochenta y cuatro de técnicos

sanitarios entre otros y por lo que he oído usted no debe ser usuaria o no sabe cómo

para construir lo que tenemos que le aseguro que no es el apocalipsis

y tiene muchos efectivos y facilita la conciliación por lo tanto por eso

formación incapacidad temporal reducciones de jornada actividades coyunturales etcétera

señora ubera se sustituye lo que se necesita es decir todo aquello que sea necesario para dar un servicio adecuado y de calidad

se ha priorizado el mantenimiento de la plantilla estructural un esfuerzo muy importante

no hemos despedido a ningún trabajador eman dizudan azalpenaren arabera

faltsuak direla ez dakit ezjakitasunez hala nahasteko borondatez zabiltzan los números que usted maneja son el resultado de sumar la plantilla estructural

porque entendemos que usted estará de acuerdo con las medidas para conciliar la vida laboral y familiar o la promoción interna mire

no le corresponde en euskadi esa bandera es de los sucesivos gobiernos que han construido
la osakidetza actual que tenemos y que parece que usted usa eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

egun on guztioi sailburuok señor consejero porque no le puedo

me llamaría al orden pero téngame que tendría muchas ganas con lo que está haciendo este gobierno con las ayudas a la conciliación

me puede usted preguntar cuando quiera señora garrido por la conciliación si es en la comisión mejor porque así haremos un comparativo con las comunidades con las que usted gobierna aquí igual no tenemos tiempo suficiente

transparencia que no podía ser de otra forma respecto a esta cámara en virtud del respeto que nos merece

sus señorías solicitan y reciben sistemática y puntualmente

incluyendo los tiempos de espera y evidentemente hasta donde se yo y como no podía ser de otra forma satisfacemos todas las peticiones que son pedidas

de hecho una de las primeras medidas adoptadas por este departamento nada más iniciar su andadura fue el compromiso de dar a conocer públicamente cada seis meses a los medios de comunicación y a la opinión pública en general el balance semestral a lo que viene a acontecer

transparencia que tanto predica este gobierno y a la que usted ha hecho referencia

porque dos acuerdos pero es que hay uno que incluso ha sido suscrito por el grupo que apoya este gobierno para que este gobierno remitiera un estudio en relación a las listas de espera

pero es que luego hay un acuerdo posterior de veintiséis de marzo de dos mil catorce en el que también se detalla el tema

que se traslade a la cámara la información detallada sobre los tiempos de las listas de espera y también que

en listas de espera o pendiente de ella pueda conocer en cualquier momento cuál es su situación concreta en las listas de espera

por el grupo que apoya a este gobierno por lo tanto no me habla de transparencia porque desde luego en este tema la transparencia brilla claramente ausencia y mire este es un tema importante porque es un tema que preocupa a la ciudadanía vasca

de medición de las listas de espera es fundamental para medir como usted bien sabe la calidad de un sistema sanitario y también

y cuando los sistemas de salud tienen que afrontar los desafíos de futuro tienen que arbitrar medidas para reducir los tiempos de listas

precisamente para que la atención sanitaria el acceso a las diferentes prestaciones sanitarias sea relativamente rápida y sea

de calidad y todos los sistemas de salud también el nuestro ha establecido medidas de garantía de tiempos máximos de espera para la atención

creo que es un motivo de preocupación de los ciudadanos pero lo que estamos viendo que lo que es un motivo de preocupación de los ciudadanos parece que no es un motivo de preocupación de este gobierno

de este gobierno viendo que no se cumplen los acuerdos de esta cámara en relación

de un sistema de información automática en relación a la remisión de la documentación y no lo están haciendo porque a petición de otra parlamentaria que también está presente en estos momentos en esta cámara ha tenido que solicitar en reiteradas ocasiones la petición de información documentada porque esas

por lo tanto no me hable de transparencia porque ustedes están incumpliendo todo lo que se refiere a la transparencia por lo menos en esta cuestión eskerrik asko

señora garrido transparencia

usted lo puede comprobar mensualmente así pues como se les viene informando

de garantía sesenta y cinco barra dos mil seis que establece los plazos máximos

y no urgentes en el sistema sanitario de euskadi y del mismo modo

se sitúa por debajo de los plazos establecidos en el plan de mejora de osakidetza de dos mil once

realizado en la pasada legislatura y que marcaba un límite de cincuenta y cinco días de espera sí se mantiene contestando nuevamente a su pregunta sobre el criterio del gobierno vasco respecto a los acuerdos parlamentarios suscritos en materia de listas de espera vuelvo a decirle que es y será